porque ha utilizado un argumento que desconoce

porque probablemente entonces tendría que cambiar el discurso mire

del coste le he

en el boletín el convenio la financiación inicial que consta

por las cosas que ha dicho es decir resulta que

en dos mil ocho se hablaba de unos ciento cincuenta y tres millónes es decir total de coste y el gobierno vasco ya sabía en aquel momento

y menos de un año después ya sabía que ese coste en dos mil nueve era de doscientos treinta y uno millónes

por redactar por hacer eso lo sabía el gobierno vasco y no se lo dijo a la diputación foral de bizkaia ambos del pnv entonces no estamos hablando de un desfase de cien millónes puesto que el coste por lo menos a falta de proyectos a redactar era de doscientos treinta y uno millónes no hay el desfase que usted dice es que no escucha no lo hay

son estimaciones de coste y que además se han confirmado luego los proyectos es decir de los cien millónes que usted habla de desfase ya hay setenta y siete o sea estamos hablando luego de veinticinco

y efectivamente ha habido obras que no estaban previstas algunas que se han incorporado y no me voy a extender porque quiero responder al señor zorrilla pero si quiere incluso después le puedo decir cuáles como la caverna de txurdinaga que fueron como unos diecisiete millónes porque hubo que moverse porque encontraron arena y se pasó a buscar roca fueron unos diecisiete millónes bien vale

sobre la marcha pero de cien millónes nada fíjese que me da igual porque quien estimó mal fue el gobierno del pnv que no dijo además a la diputación lo que había

voluntad política mire voluntad política

voluntad política es que el gobierno vasco y la diputación foral de bizkaia que el pnv haga las modificaciones presupuestarias

para cumplir las obras en dos mil dieciséis porque con lo que tienen previsto ambas administraciones no se cumple

y dígame voluntad política cuántos proyecto de los que quedaron redactados al final del anterior gobierno para licitar se ha licitado hasta hoy cinco meses después porque están la obras prácticamente paradas

cinco meses sin hacer nada dónde está la voluntad política de avanzar cuántos proyectos ha licitado pregunten a la consejera este gobierno cuántos ha licitado de los que hay hecho

la obra civil no es la versión de cada uno son los datos

no se ha acabado la obra y los retrasos provienen de desconfianzas entre la diputación foral de bizkaia el señor bilbao

y la consejería del departamento del momento y dice usted que

que tiene un departamento que le puede dar todos en dos mil diez se ejecutaron veinticuatro coma seis millónes gobierno socialista porque en dos mil ocho no se ejecutó nada en dos mil nueve

a partir de mayo dos mil diez veinticuatro coma seis millónes dos mil once treinta y ocho coma ocho

foral cumplió y dos mil doce veinticuatro coma tres menos y se pidió públicamente y a la diputación en la comisión de seguimiento que atendiera los compromisos establecidos que era para acabar en plazo un promedio de cuarenta millónes anuales

en dos mil doce dijo que no ponía lo que le tocaba solo lo establecido

tampoco importaba el avanzar en las obras tampoco importaba lo que querían era ese año asfixiar al gobierno socialista que mantuvo todas las obras abiertas poniendo dinero

e invirtió veinticuatro coma tres millónes es falso lo que usted dice menos

voluntad es impresionante porque una cosa mire yo entiendo que cada uno tiene que defender su gobierno sus propuestas su política pero puede hacerlo no diciendo cosas pero lo que no puede hacer es mentir como acaba de hacer usted

el retraso se debe a desencuentros y engaños entre las dos administraciones del pnv

a cinco millónes de parón que llevamos ahora mismo y cuando avanzó la obra

es en los dos años que le digo de la legislatura pasada solo que espero entonces que haya el compromiso de aquí al dos mil dieciséis los treinta y siete millónes y medio que entre las dos administraciones al cincuenta por ciento tienen que poner para que se acaben las obras en ese plazo

lo van a hacer porque llevan cinco meses sin hacerlo y el año corre lo van a hacer

como decía al comienzo de mi exposición en mi primer turno repasando hemeroteca desde la sexta legislatura hay muchas iniciativas referidas a la línea tres del metro y muchas he de reconocer que son del grupo popular

lo que me sorprende es que durante la novena legislatura únicamente aparecen sobre este tema varias preguntas

y ninguna iniciativa del grupo popular me imagino que algo tendría que ver su relación de consorte con el gobierno socialista

y cumplir plazos para que hoy pudiéramos estar más cerca del final de las obras

y no hubiese sido necesaria la aprobación de esta propuesta respecto al señor reyes bueno pues yo

es quien no da todos los datos y bueno usted ha hecho una exposición de la ejecución de lo previsto en el plan de financiación de dos mil ocho al dos mil once

un treinta y ocho por ciento en el dos mil diez ejecutaron veinticuatro pero no ha dicho que de cuarenta y tres que había previsto eso en el convenio un cincuenta y cinco por ciento

sí que como hemos dicho en el dos mil doce hubo ese tirón que ya vuelvo a decir a qué fue debido entonces hay que decir todo si se hizo lo ejecutado también lo previsto y si se hubiera

hoy la fase de obras probablemente podríamos decir que están más próximas es curioso

poner fechas y el cumplimiento de plazos y por decir en esa hemeroteca en ese repaso de la noveno legislatura preguntas de la parlamentaria

el señor consejero decía que la estación de san antonio sería adjudicada ese año en el dos mil nueve y ejecutada a lo largo del dos mil diez y dos mil once pues fue adjudicada

todavía no está terminada la ejecución de dos mil diez dos mil once dos mil doce no llegaba ni con mucho a la mitad de lo presupuestado porque hubo

subió a diez millónes doscientos sesenta y tres mil luego explicaremos algunos de estos cambios que también ha hecho referencia la señora beitialarrangoitia luego ya pues

no estaba tan previsto porque a preguntas el dieciocho de marzo del dos mil once de la parlamentaria señora amaia arregi qué nueva fecha barajan para la nueva apuesta en marcha de la línea tres

el catorce de octubre del dos mil once a preguntas del parlamentario juan antonio arieta araunabeña cuál es la previsión de entrada

el consejero no sabe no contesta si tal y como estaba previsto y tan estaban tan

ha expuesto claramente cuál es la situación de la obra cuáles son los plazos reales y como he dicho hemos

se pueda completar hablaba la señora beitialarrangoitia de caprichos el tema de la automatización del sistema del metro no estaba recogido en el convenio tampoco estaba el cambio de gestor

parece que se hicieron actuaciones y esas actuaciones supusieron como ha dicho cuatro millónes novecientos mil euros

a los doscientos setenta y siete además de esa indefinición lo que supuso fue un retraso evidente

que afrontar y como decía el señor reyes cada uno pues tiene que defender su gobierno su política su gestión y usted la verdad es que tiene un autentico papelón

la ejecución que el gobierno socialista ha hecho en los tres últimos años y medio pues a mí me daría

el presentar una proposición para que otros a exigir a otros que hagan lo que no hemos hecho nosotros
no tenga dudas que nosotros si asumimos un compromiso lo cumplimos y aquí estamos hablando de destinar una pequeña parte mesedez isiltasuna hitz egiten ari da eta de ese

a la obra de la línea tres del metro también podían en esos tres años y medio en el que han estado gobernando y nos han endeudado por un importe superior a los seis mil quinientos millónes de euros

tampoco hoy estaríamos hablando aquí de este tema para finalizar quiero terminar con un mensaje positivo bukatzeko gauza bat argi eta garbi esan nahi dugu

y compromiso con la línea tres del metro bilbao compromiso seriedad y rigor y por ello lo que queremos es trasladar a los vecinos afectados de txurdinaga otxarkoaga

que las obras van a realizarse de la mejor manera posible y van a finalizar lo antes posible poniendo todo el empeño

al grupo socialistas vascos nos preocupa que uno de los próximos objetivos del señor rajoy del gobierno de españa y del partido popular

de las infraestructuras y servicios de transporte como por ejemplo aena renfe etcétera

que la intención de su gobierno es la de aprobar la liberalización de determinados servicios entre los que citó la gestión de infraestructuras y servicios de transporte para supuestamente

para que sean mucho más económicos para los ciudadanos pero todos sabemos que la privatización del transporte no es una solución no va a producir esos objetivos que pretenden buscar

ni va a solucionar los supuestos problemas por los que pretenden producir su privatización

que han realizado otros países que solo pueden considerarse como experiencias nefastas y resaltamos algunas de ellas

el gobierno privatizó los servicios de ferrocarril y transbordadores en mil novecientos noventa despojando los compradores a estos sectores de todos los activos vendibles en dos mil ocho el gobierno no tuvo más remedio que volver a poner bajo control estatal un transporte y que seguía produciendo pérdidas o el caso de inglaterra en mil novecientos noventa y cuatro el último año de funcionamiento de la empresa estatal de ferrocarriles costó a los contribuyentes novecientos cincuenta millónes de libras en dos mil ocho la red de ferrocarriles su sucesora

costó a los contribuyentes cinco billones de libras aparte de este dato se comprobó que el transporte público perdió cuota

que el número de reclamaciones aumentó exponencialmente llegando hasta

al año y que la percepción de los usuarios sobre el servicio que se deterioraba en relación a las dos

variables del servicio la fiabilidad y la puntualidad ello sin mencionar

y los desafortunados accidentes ferroviarios que se produjeron otro ejemplo es el caso del metro

para invitar a los inversores interesados a participar se aseguró a las compañías compradoras que pasara lo que pasara estarían protegidas a las pérdidas graves en este sentido se puede señalar que el sector privado se embolsaba los beneficios

al estado el transporte público es un sector necesariamente deficitario puesto que su finalidad

en consecuencia privatizarlo solo puede conducir a dos cosas la reducción de servicios para intentar llegar a la rentabilidad económica necesaria en cualquier tipo de empresa

los activos que son de todos los trenes los túneles las instalaciones a manos privadas para que todos sigamos pagando por ellos tanto directamente vía

vayan a los bolsillos de unos pocos en lugar de contribuir al sostenimiento del servicio

el problema a la hora de privatizar servicios esenciales para la población como el transporte es que nunca podría permitirse que estos servicios nacionales quiebren

sabedores de que el gobierno acudirá a su rescate en el caso

de los que los estados tratan de desprenderse han sido mal gestionados por incompetencia

no obstante por mala que sea la gestión los servicios postales las redes ferroviarias

privatización no pueden dejarse por completo a capricho del mercado en la gran mayoría de los casos son el tipo de actividad

regular por eso acabaron en manos públicas en su momento es bien sabido que la disminución de servicios públicos tiene consecuencias negativas sobre una sociedad

no conducen a un mayor crecimiento económico a largo plazo pero además

la brecha entre ricos y pobres en consecuencia la privatización de los sistemas de transporte en españa no traerá más riqueza al país al contrario agravará la brecha entre ricos y pobres a parte de encarecer dichos servicios pero como consecuencia lógica de este hecho los beneficios repercutirán en los accionistas de dichas empresas

por servicios de los que no se puede prescindir sin embargo quizá el mayor daño se presenta

y que es la pérdida de la identidad de servicio público como tal ya que cuando

la noción de que todo el mundo tiene derecho a utilizarlo se erosiona

el servicio público representa una conquista para los trabajadores y sus familias y de algún modo muestra la posibilidad

sobre las personas y las necesidades sociales y no

de transporte de titularidad del gobierno de españa y apostar y mostrar nuestro parecer favorable a su mantenimiento como servicios públicos instando al gobierno vasco

mariano rajoy y no solo eso sino que también defienda el empleo existente en estos servicios

mostrando su postura contraria a la pérdida de los mismos o incluso su precarización muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna

cuatro barra dos mil trece de veintidós de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y estimulo del crecimiento y la creación de empleo sin previa justificación

establece determinadas cuestiones que afectan al ámbito ferroviario y que son claras incumplidoras de las competencias que por ley corresponden a euskadi

empleando el criterio de territorialidad como lo hace el estatuto de autonomía en su artículo diez punto treinta y dos

se entiende por lo tanto que las líneas al estar interconectadas formando una red y para determinar la titularidad competencial debe estarse en la utilización

cuando se discutió esta cuestión en cataluña cuando hablamos de transferencia de ferrocarriles hablamos tanto de criterio territorial como el de la infraestructura en sí el tribunal constitucional establece que el itinerario del que se habla es el de la infraestructura y no el de los vehículos que se desplazan sobre las vías férreas carreteras o caminos y volviendo al real decreto ley cuatro barra dos mil trece este que invade competencias que por ley le corresponden a esta comunidad este precepto legal no respeta

el artículo treinta y ocho y anexo recoge un catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general del estado que vulnera las competencias de euskadi en materia de ferrocarriles en dicho catálogo se incluyen todas las líneas que discurren por la comunidad autónoma vasca esta catalogación de líneas como de interés general

al futuro de la transferencia recogida en el estatuto de autonomía la sentencia ciento dieciocho barra ciento noventa y seis del tribunal constitucional señala que solo excepcionalmente podrán invocarse razones de interés general

que transcurran por una comunidad autónoma puesto que es contrario a la distribución de competencias que marca la propia constitución y cuando hablamos de interés general hablamos de interés general

se trata de once líneas y tramos de las que seis transcurren íntegramente por territorio de la comunidad como la línea ciento seis a irún

la setecientos ochenta y dos entre ariz y basurto hospital y la setecientos ochenta y cuatro entre lutxana barakaldo

líneas que desde el gobierno vasco y desde este parlamento se ha exigido su transferencia

también denunciamos la falta de transparencia y lealtad institucional ya que esta maniobra se ha hecho de manera encubierta a través de un real decreto ley sobre medidas económicas ajeno a la materia de ferrocarriles por todo ello

la inclusión de estas líneas y si el gobierno español no aceptara su negociación

y en relación a la anunciada privatización de algunos puertos del estado para conseguir ingresos extraordinarios y en relación con el puerto de bilbao que parece ser que aparece en la citada relación según algunos medios de comunicación el puerto de bilbao como el de pasaia son puertos de interés general

son competencia exclusiva del estado eso sí la posible privatización

y en consecuencia la pérdida de la condición de interés general comportaría el cambio de su titularidad a favor de la comunidad autónoma vasca

tiene competencia exclusiva en materia de puertos siempre que no estén clasificados como de interés general si el estado

exigimos que se traspase la competencia de aquellas infraestructuras que por ley orgánica son nuestras y además entendemos que dejan de ser infraestructuras y servicios públicos de interés general para el estado no para la comunidad hori bai

buenos días señorías tengo

eh bildu nos asaltó una extrañeza enorme primero porque

tanta bandera contra las macroinfraestructuras se mostraran tan preocupadas por su futuro algo sorprende segundo porque quienes tanto desdeñan

de quien ni tan siquiera reconocen y en tercer lugar

ni la situación descrita se corresponden tampoco ahora tampoco en esta proposición no de ley con la realidad por mucho que el resto de grupos parlamentarios hayan entrado al juego planteado por eh bildu como ustedes saben nuestro país atraviesa y esto no es insisto ningún descubrimiento

más complicado desde un punto de vista económico de su historia reciente el momento más complicado de su historia reciente y también lógicamente

los poderes públicos administrados de una manera racional pretenden optimizar o deben de optimizar los recursos para mantener unos estándares mínimos

el mundo ha cambiado y lo que antes solo se podía ofrecer a través de la gestión directa por parte de los poderes públicos afortunadamente hoy afortunadamente ahora encuentra y recomienda nuevas formas nuevas fórmulas de gestión

público privada colaboración público privada y además ha cambiado tanto el mundo que ya no solo depende de nuestros intereses o de nuestra voluntad

de eso dependiera el mantenimiento de los monopolios públicos sino que la unión europea europa aprueba directivas

con el objetivo indisimulado de mejorar la diversidad de la oferta

de la que siempre a más diversidad a más oferta se benefician quién efectivamente el ciudadano por ejemplo

el libro blanco de la unión europea aprobado por la comisión

nace con el pretexto de mejorar la red de transporte europeo y entre los objetivos que promulga

ferroviario integrado eficaz y de total y libre competitividad y de total competitividad porque en la actualidad los operadores públicos nacionales ejercen un monopolio absoluto

en las que se encuentran por cierto dentro de su dominio público y por lo tanto imposibles de privatizar

que se confunden espero que no intencionadamente si no por desconocimiento

una política de escasa transparencia por un lado en cuanto a la publicación y justificación de costes por ejemplo de rendimiento de resultados por ejemplo

y concede la posibilidad de aplicar unas tarifas únicas y carentes de competencia de lo que como ustedes también deducirán quién sale perjudicado

dice que la deseada liberación permitirá la incorporación de nuevos operadores

a lo largo de la red tanto nacional como internacional fomentando así

la rivalidad entre operadores que tendrá ahora que luchar por conseguir cuota de mercado y el principal beneficiario será el cliente que verá sus posibilidades de transporte algo a lo que al parecer ustedes se oponen esto empezando por lo poco real de la proposición no de ley planteada por eh bildu pero entremos en la parte que tiene de realidad o la parte que tiene de verosimilitud lo planteado por eh bildu

como ustedes saben aena está en un proceso de privatización parcial de determinados servicios de determinados

y según anunció la ministra de fomento la voluntad del gobierno es cierto

lo que supondrá la obtención de recursos económicos el mantenimiento de servicio

por cierto manteniendo la mayoría del capital en manos del estado es decir

seguirá siendo mayoritaria estatal saben ustedes por qué se toma esta decisión entre otras cosas conocen ustedes la deuda de aena

millónes de euros aena sociedad pública estatal

de euros sin solución de continuidad y lo que ustedes nos plantean es que nada cambie que la deuda siga engordando y que los ciudadanos sigan pagando una gestión

pero desde luego que no da buenos resultados aena va a seguir siendo

pública aena va a seguir siendo controlada por los poderes públicos pero con la venta del cuarenta y nueve por ciento de su capital se pretende reducir esa

millónes de euros y es verdad que hay dos modelos o continuar como estamos hasta ahora o introducir

en aquellos servicios que no afectan al

hasta aquí la parte la pequeña parte de realidad

en renfe ya es el despropósito absoluto renfe tiene previsto dividirse en cuatro sociedades cuatro sociedades públicas y se está tramitando es cierto

recorrido no se habla por cierto de líneas de cercanías como se afirma equivocadamente quiero entender en la proposición no de ley hoy propuesta

se les va a ofrecer la posibilidad de utilizar las líneas de largo recorrido en horario diferente al que utiliza

renfe por ejemplo no se va a privatizar la línea de la alta velocidad

pero se va a permitir que en los horarios en los que renfe

pueda entrar un operador privado a competir con renfe

qué tremendo para el ciudadano verdad que allí donde renfe no opera entren a competir particulares a ofrecer un servicio complementario

equivocadamente no sé con qué en base a qué mezclan liberalizar con privatizar y renfe para empezar no se va a privatizar las líneas por donde

no se pueden privatizar se va a liberalizar el servicio para que puedan introducirse para que puedan entrar operadores a competir con renfe primero

mejora el servicio prestado al ciudadano ofrece más posibilidades al ciudadano

porque nos obliga la unión europea porque estamos en europa y porque se liberaliza el servicio y es lo que tiene la libertad y es lo que tiene

al ciudadano más allá de dogmas ideológicos o de posiciones poco entendibles y claro cuando se dice y he tomado nota literalmente de dónde se han sacado ustedes eso que se va a privatizar la línea bilbao muskiz bilbao santurce

de líneas de cercanías cuando es materialmente imposible como se lo he dicho

a quién se pretende asustar qué mensaje se pretende transmitir a los ciudadanos

ante este despropósito y termino ya señora presidenta obviamente el grupo parlamentario popular va a votar en contra de todas las iniciativas presentadas hoy en este pleno gracias

eta lan baldintzak eta eskubideak errespetatu behar dira la excusa no puede ser que el transporte no es rentable

no se puede tener como criterio la rentabilidad en los servicios públicos no nos podemos fijar en la cuenta de resultados o en una rentabilidad económica

porque necesitamos tener competencia en los dos ámbitos en la gestión del servicio pero también en la gestión de infraestructuras

de infraestructuras de transporte de su competencia en euskadi de acuerdo a criterios de calidad igualdad fiabilidad y seguridad y por último defendemos

muchas gracias señora presidenta me alegro que la mayoría de los grupos representados en esta cámara que han intervenido

usted dice y ha querido vendernos aquí

van a ser los ciudadanos cuando saben que eso no es verdad que los únicos que se van a beneficiar son las empresas

va a repercutir en el servicio no sabemos que no por lo tanto

de esta privatización y habla usted si conocemos o sabemos cuál es la deuda que tiene pues claro que la conocemos pero dígame usted a mí qué servicio público no es deficitario cuál tiene beneficios ninguno porque la intención

satisfacer las necesidades de la sociedad y las administraciones asumimos que priorizamos el cubrir esas necesidades y asumir

es aquel que prioriza el beneficio empresarial en vez de los intereses ciudadanos pero bueno de todas maneras

no estamos de acuerdo que la solución para el mantenimiento de los servicios públicos del transporte parta de la solicitud del traspaso de las competencias pendientes en dicha materia los socialistas estamos de acuerdo en la transferencia de competencias del artículo diez punto treinta y dos del estatuto que quedan pendientes

en virtud deese artículo que invoca expresamente el artículo ciento cuarenta y nueve punto uno punto veinte de la constitución española

ni ostentaría competencia alguna sobre los puertos y aeropuertos de interés general ni sobre las redes de transporte que atraviesa más de una comunidad autónoma ni qué decir tiene de las redes transeuropeas que atraviesan más de un estado miembro de la unión europea es precisamente en relación a estas infraestructuras

y redes de transporte que atraviesan más de una comunidad autónoma donde los socialistas vascos solicitamos la participación de los gobiernos autonómicos eso sí

de la eficiencia de los recursos y desde la gobernanza es decir

a partir de una visión compartida de la movilidad y las infraestructuras eso es precisamente lo que reflejamos en el punto número tres de nuestra enmienda no podemos estar de acuerdo en la transferencia sin más de las infraestructuras portuarias ferroviarias y aeroportuarias creemos sinceramente

indeologizados y poco prácticos que a un análisis serio y sensato sobre qué es lo que más conviene a la sociedad

además de garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos de todos

deben de hacerlo desde una visión compartida de la movilidad de nuestro territorio en este sentido

a partir de esquemas de gobernanza como los impulsados por el anterior gobierno socialista de integrar a todos los operadores concernidos en las

y ya tuvimos ocasión de preguntar a la consejera en su momento cuando anunció que iba a pedir la transferencia de los puertos y aeropuertos alguien se ha preguntado cuánto cuesta esas infraestructuras y su mantenimiento y su déficit de explotación cuánto es cuánto va a suponer para las arcas vascas esta asunción de verdad

va a ser como las transferencias políticas activas de empleo que nos cuesta aquí cuarenta millónes de euros más

es uno de los gestores aeroportuarios más reconocidos del mundo ello se debe a que cuenta con técnicos altamente cualificados

cuyas labores y costes se encuentran perfectamente justificados al tener que prestar un servicio a una red de más de cuarenta aeropuertos en españa vamos a tener que montar

contratar todos los técnicos precisos para dar servicio a tres aeropuertos en la actualidad hay servicios que son prestados por unos pocos técnicos no más de tres de aena que dan servicio a toda la red española de aeropuertos

a esos tres técnicos también para los tres aeropuertos de euskadi

y de las infraestructuras ferroviarias sino se diga que el gobierno vasco cuánto nos cuesta

en estos nuevos tiempos es posibilitar modelos de gobernanza que a partir de una visión compartida de la movilidad en euskadi permita a las instituciones vascas gestionar todos aquellos aspectos

en un mejor servicio para la ciudadanía en relación a la enmienda transaccional presentada por pnv y eh bildu decir que solicitamos en estos momentos la votación por puntos ya que estamos a favor del punto número dos y del número tres pero votaremos la abstención sobre el punto uno porque nos parece insuficiente como lo acabo de trasladar

la constitución dice que los puertos y aeropuertos son de interés general y no se nos va a transferir
desde el partido socialista creemos que tenemos que buscar esas vías para que también el gobierno vasco pueda tomar decisiones respecto a ellos muchas gracias eskerrik asko

geurera etortzeko hori da egiten dugun irakurketa siguiendo con el señor zaballos usted dice que la enmienda de transacción el punto uno que es insuficiente y que

y que el gobierno vasco anterior hizo defensa del estatuto de autonomía eso es lo que tendría que haber hecho por lo tanto no reclamó la transferencia

el estatuto de autonomía del país vasco porque ustedes hoy son incapaces de votarla

por puntos porque son incapaces de solicitar el cumplimiento íntegro del estatuto de autonomía del país vasco aquel al que se le ha dedicado un día

para fiestas sí para cumplimientos no eta nik gauza bat argitzearren

no estamos en contra de ello pero sí creemos que hay que defender y hay que garantizar el carácter público de los servicios de transporte
en eso sí estamos de acuerdo mila esker eskerrik asko

gracias señora presidenta señor erkoreka vaya papelón que tiene usted aquí
teniendo que ver cómo su grupo parlamentario pacta con eh bildu tan descabellado

los puestos de trabajo solo se pueden mantener si el servicio se puede seguir manteniendo mire los puestos de trabajo solo se pueden mantener si es materialmente posible

que el empleo y los puestos de trabajo solo se pueden mantener si la gestión es eficaz si hay dinero para mantenerlos el problema está que con este saco sin fondo va a llegar un momento

y con esas actitudes quienes salen perjudicados son los trabajadores el no hacer nada el quedarse quieto para que todo siga igual no funciona no da respuestas hay que actuar

eso es el abc de la gestión en este caso

yo no he venido aquí a venderle absolutamente nada he venido a contarle una realidad una realidad por un lado que es la unión europea lo que usted no ha hecho ni tan siquiera mención

hay que liberalizar el servicio que no supone ninguna privatización y mucho menos de ningún servicio prestado por renfe es el mantenimiento de renfe y la entrada de nuevos operadores a competir con renfe

y lo que va proporcionar un servicio mejor al ciudadano

en un discurso sorprendentemente bolivariano también cuando

no le gusta decía los únicos que se van a beneficiar de la liberalización son las empresas

en nuestra sociedad quién crea puestos de trabajo las empresas quiénes se benefician de la libre competencia

más empresas compitiendo para ofrecer el mismo servicio los ciudadanos por lo tanto si la liberalización por un lado genera puestos de trabajo y por otro lado beneficia al ciudadano

ese discurso que ustedes manejan el dinero es del aire es del viento no es de nadie y efectivamente hay muchos servicios públicos que son deficitarios que son servicios subvencionados pero catorce mil millónes de euros

que hay que seguir sin que cambie engordando y engordando el déficit hasta dónde cuál es el límite

cuando no haya capacidad material de sustentar ninguna sociedad pública porque todas

pero de qué estamos hablando qué mensaje se quiere transmitir a la ciudadanía ustedes si quieren sigan con sus discursos no voy a decir bolivarianos porque no les gusta

pseudoideológicos sigan con sus peleas de transferencias de quién es quién de si es del padre de la madre

nosotros seguiremos intentando solucionar este desaguisado

el servicio que prestamos al ciudadano alejados de discursos de mítines y muy cercanos a una gestión por cierto eficaz no paga usted

pagan los ciudadanos con sus impuestos y esos a los que debemos una gestión eficaz

y señores parlamentarios cuando se presenta una iniciativa en esta cámara normalmente en el registro se le suele dar un título en este caso el título de la

iniciativa que nos ocupa es en relación con las auditorías del gobierno vasco y si yo tuviera que poner título a esta iniciativa que presentamos la titularía de la siguiente manera al gobierno vasco

le sobra una auditoría y a la ciudadanía le faltan

esta iniciativa el uno de enero del año dos mil doce el señor egibar acusó al gobierno vasco de guardar facturas en el cajón

mesedez isiltasuna que no era capaz de controlar incluso

que se había dado una orden para que esto se hiciera así el diecinueve de enero del mismo año el diputado de hacienda de bizkaia señor iruarrizaga emplazó al lehendakari patxi lópez a explicar sus cuentas públicas su situación de déficit y su endeudamiento

que la situación del ejecutivo era de emergencia y advertía del riesgo de quiebra inminente

las cuentas del entonces gobierno vasco se escondía un cuadro de déficit desbocado y de falta de recursos y añadió que se había llegado al límite

desesperada del gobierno para pedir ayuda porque tenía las arcas vacías

precisó que euskadi en absoluto estaba en quiebra pero esto tampoco lo tomó en consideración

pocos días después el señor urkullu insistía en su particular percepción

era la de pan para hoy y hambre para mañana refiriéndose a la política de más deuda y más impuestos justamente la que hoy preconiza

cuando reclama la flexibilización del déficit cuando se endeuda o cuando quiere hablar de fiscalidad

aunque le salió otra cosa no es lo mismo estar fastidiado que estar fastidiando

el señor ortuzar acusó de falta de transparencia al ejecutivo y pidió que se dijera la verdad en esas mismas fechas el consejero de hacienda y economía señor aguirre explicó que la liquidación del ejercicio

incorporaba todos los gastos que no había facturas en el cajón que el saldo de las cuentas a treinta y uno de diciembre del año dos mil once

que a treinta y uno de enero de dos mil doce era de seiscientos veintisiete y que sumando la tesorería de las empresas y sociedades públicas

de liquidez todo esto en un escenario de recaudación efectuado por las diputaciones forales de

es decir con mil veinte millónes menos

también el señor aguirre en aquella ocasión explicó que en eso días teníamos autorizada y estamos hablando de principios

una primera emisión de deuda de cuatrocientos cuarenta millónes que el endeudamiento de euskadi era el más bajo de todas las administraciones españolas

representaban poco más del dos por ciento del presupuesto como se podrá comprobar todo daba igual el objetivo del partido nacionalista vasco

de modificar su estrategia alarmista el señor urkullu estaba lanzado y el perfil de mesura

hace solo unos meses no le resultaba conveniente le costase al país lo que le costase el partido nacionalista vasco no podía permitir que la realidad que la verdad que la información le desviará de su afán por dañar al gobierno aunque sobre todo

o como cada cual quiera llamarle a nuestras expectativas y necesidades financieras o a las relaciones económicas y comerciales del país vasco en el exterior así en junio el diputado general de bizkaia volvía a la carga insistía en la misma cantinela

a continuación el intrépido ortuzar en julio decía

afirmaba que estaba en números rojos y que el partido nacionalista vasco daría la vuelta a la situación al día siguiente de ganar las elecciones porque euskadi no estaba para perder

como el capitán araña él se ha ido y se ha llevado las soluciones que tenía para el día después de ocupar el gobierno y les ha dejado a ustedes aquí solos perdidos

sin debate presupuestario y convocando asambleas de parlamentarios y afines fuera de aquí para evitar al parlamento y quizás para que pueda acudir a ellas el señor ortuzar y con él seguimos con el señor ortuzar porque fue

el que insistió en que no se contaba qué agujero existía y que las facturas en vez de pagarse a noventa días se pagaban a doscientos

con sus distintos portavoces estuvo tratando de crear un caldo de cultivo para la confusión y la sospecha sobre las cuentas y los procederes del gobierno y así llegamos

considerando que ya había calentado suficientemente el ambiente tenía algo que anunciar y nos anunció que instaba a someter a las cuentas

para reforzar el ejercicio de sinceridad de los órganos internos del gobierno autónomo el dieciocho de octubre

y la solemnidad y le dice al lehendakari lópez que no se irá de rositas

rota y destrozada y que pedirá una auditoría independiente desde el primer día que acceda al gobierno la verdad es que esto que se dijo

porque urkullu esperó algunas semanas antes de pedir la auditoría

porque mientras tanto nos enviaron desde el partido nacionalista vasco algunos recados para que nos portáramos bien y así no habría que mirar a nuestro pasado más reciente

los recados del pnv porque la auditoría se encargó aunque por poner las cosas en su sitio el lehendakari tampoco entendió el recado

y es que si tenía mucho empeño incluso capricho con la auditoría se la pagara de su bolsillo

en el mes de marzo el gobierno da a conocer la auditoría auditoría que cuesta a los contribuyentes

que la propia administración le facilita porque estaba preparada y era pública

en diversos momentos por el gobierno vasco anterior para este resultado es de lamentar que ni al señor

una caja con tesorería una notable capacidad de endeudamiento

tampoco le sirvió disponer de los medios de la administración para comprobar datos y desde luego que no le sirvieron los funcionarios que curiosamente sí sirvieron a los auditores

al que hicimos apelación en reiteradas ocasiones si se quería

el señor urkullu estaba empecinado en la auditoría externa la hizo la hizo para nada salvo para mal gastar veinte mil euros pero la hizo

y porque así hemos llegado hasta aquí queremos poner remedio a esta manera de improvisar de inventar de inventar situaciones falsas para acabar malgastando dinero público este gasto de veinte mil euros ha sido totalmente

e injustificado porque se ha pronunciado sobre lo que estaba a la vista de todos y sobre lo que era fácilmente comprobable por los propios funcionarios

es un buen exponente de lo que no hay que hacer en la administración pública mediante la decisión política que es en este caso

y gastar recursos contra el interés público para evitarlo en el futuro los socialistas proponemos que este parlamento resuelva que si hay que hacer auditorías

y con el tribunal vasco de cuentas y también proponemos que si fuera necesario acudir a servicios externos se valore y se decida en el parlamento

añado que estamos de acuerdo con las precisiones que quiere incorporar bildu y que si se somete a votación las apoyaremos por último y porque me parece de justicia

irekia para actuar como gobierno abierto en lo que a transparencia y participación se refiere que en diciembre del dos mil nueve se ordenó el inicio del proyecto de apertura de los datos públicos

y con una directiva europea que era de dos mil tres para la reutilización de la información del sector público en favor del desarrollo económico que en septiembre del dos mil diez se presentó el perfil del contratante que lo demandaba también una ley del año dos mil siete

se conocieran las convocatorias de licitaciones y sus resultados y la información relevante que en relación

se hiciera desde los poderes públicos en noviembre del año dos mil doce el gobierno vasco fue reconocido por la organización transparencia internacional como el más transparente de los gobiernos de comunidades autónomas

en las relaciones con los ciudadanos la sociedad el área económica financiera la contratación de servicios obras y suministros en febrero

opendata fue elegido en el congreso nacional de interoperabilidad y seguridad como el mejor portal público de españa en transparencia de datos recibiendo el premio proyecto referente en transparencia en administración central autonómica o local es obvio que todo es mejorable

lo ha logrado más bien y lamentándolo las herramientas de transparencia tan reconocidas con el anterior gobierno ahora están sufriendo bastante

política de dicho abandono y también por esto creemos que estamos cargados de razón para que a partir de aquí estas cosas se puedan hacer como proponemos en nuestra pnl y por eso les invitamos

tras escuchar la intervención

a la conclusión que he llegado es que este va a ser un debate de competencia entre dos grupos políticos para

o quién está haciendo más en el caso de la transparencia y de las auditorías y poco va a tener que ver este debate con lo que realmente se ponía en la proposición no de ley que era hablar de lo que supone las auditorías externas en el fondo

son las que se ponen en duda a la hora de acceder a unas auditorías externas yo por mi parte centraré el discurso en lo que realmente proponía esa proposición no de ley y

y que votaremos a favor porque entendemos que es la mejor manera de poder votar la enmienda que realizamos nosotros y que pueda salir adelante

en la propuesta del pse se cita la necesidad de reforzar el ente público de control

y auditoras externas y todas ellas de carácter privado y en la mayoría de los casos multinacionales de consultoría y de auditoría y encima

por omisión de responsabilidad o por ser parte

además en este momento en el que todo el sector público y sus trabajadores están cuestionados es necesario avalar y controlar todo lo que pueda ser un servicio paralelo a los servicios que se prestan o se pueden prestar por los y las trabajadoras públicas de otra manera lo que se está realizando no deja de ser un progresivo debilitamiento de lo público

alegando mejoras en los costes y en la gestión misma o en palabras habituales en esta cámara control del gasto público y lo que hay que controlar

tanto de trabajar en la empresa privada como yo de aeronáutica

cita también un apunte que nos parece imprescindible como es la necesidad de una ley de transparencia que aborde el acceso libre a la información pero también por parte de la ciudadanía

contrataciones dudosas etcétera permitir un acceso real a los contratos y al gasto realizado por parte de los entes públicos en su actividad

poner en valor los organismos públicos de control internos que existen dentro de la administración pública bestetik euskal herria bildutik proposatzen genuen talde sozialistak proposatutako bigarren puntua aldatzea eta horrela geratzea para el supuesto de que excepcionalmente y remarco excepcionalmente se recurra a servicios externos para la realización de las auditorías el parlamento vasco insta al gobierno vasco

al mismo parlamento vasco a fin de que este exprese su opinión junto con la notificación se enviará un presupuesto detallado y riguroso del servicio externo

por un lado creemos que es importante mantener el carácter de excepcionalidad de la búsqueda de auditorías externas para dar un mayor peso a los órganos públicos que realizan ese trabajo y que merecen un mayor reconocimiento tanto por su labor diaria como por su profesionalidad por otro lado nos parece irrenunciable que la realización de estas auditorías externas pase primero por sede parlamentaria

y que se presente un presupuesto detallado del coste de estas auditorías aquí en el parlamento estamos acostumbrados a hablar de miles de euros con cierta frivolidad

en qué se traducen las decisiones políticas que tomamos cuando las pasamos a euros esto es control del gasto y no

y los trabajadores públicos seguramente no podrá ser aprobada nuestra propuesta de enmienda al segundo de los puntos pero en conciencia y en coherencia votaremos la opción menos mala esperemos que otros grupos también hagan lo mismo con nuestra iniciativa

señor prieto es la política de no gastar más de lo que se tiene esa es

una idea clave para empezar nuestra exposición señoras y señores parlamentarios hoy debatimos una iniciativa absurda señor prieto

acaso no hace el partido socialista de euskadi análisis auditorías informes en aquellas instituciones en las que gobierna

qué es lo que pretenden ustedes que el gobierno no pueda ni siquiera contratar según lo establecido en la ley ese es el objeto de esta iniciativa

brevemente a analizar incorrecciones en la justificación de su iniciativa el trabajo realizado

en este caso los auditores no expresan una opinión sino que informan sobre la situación de deuda y de los créditos comprometidos

general del país vasco de las sociedades organismos autónomos fundaciones entes como bien habrá podido leer usted señor prieto en el informe que a esta cámara se ha remitido en respuesta

realizada por su grupo parlamentario en ese informe dice expresamente no expresamos una opinión sobre el objeto de nuestro trabajo en la justificación de la iniciativa también dice usted aquella auditoría

ya había acreditado por lo que el gasto no queda justificado

señor prieto es mucho decir y maldecir

que entre la información analizada por la firma como se detalla en el mismo informe está el informe de fiscalización del tribunal vasco de cuentas públicas del año dos mil diez pero no así el del dos mil once y dos mil doce porque no están hechos esos informes de fiscalización esos dos ejercicios también

han sido analizados por la firma auditora y saben perfectamente que no dispondremos del informe de fiscalización correspondiente al ejercicio

hasta bien entrado dos mil catorce por otra parte es importante destacar también que el tribunal vasco de cuentas públicas realiza este tipo de informes

pero no de todos los organismos autónomos sociedades entes y fundaciones como lo ha hecho en este caso la empresa auditora vamos a ir argumentando lo absurdo de la iniciativa ahora desde la perspectiva jurídica

económico y contabilidad de la comunidad autónoma de euskadi establece

de empresas externas para ejercer la labor de control económico financiero corriente que corresponde a la oficina de control económico dice exactamente

asimismo podrá servirse de medios ajenos a la propia administración contratados al efecto cuando se refiere al ejercicio de control económico financiero y de gestión el artículo diecinueve de la misma ley catorce barra mil novecientos noventa y cuatro dice que podrán referirse

en informes de control financiero que podrán referirse a la totalidad de la gestión económico financiera del sujeto controlado o a una parte de ella en el periodo considerado

utilizar y en su caso incorporar y hacer suyos los informes elaborados por otros órganos de control o por auditores externos

el artículo ciento veintidós y en relación con el procedimiento de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas dice

a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria y dice que se consideran contratos menores los contratos de importe inferior

cuando se trate de otros contratos dieciseis mil quinientos era en coste del informe

ustedes en su grupo parlamentario como nosotras en nuestro grupo parlamentario

un documento sobre auditoría pública destacaré algunas ideas relacionadas con la iniciativa que hoy debatimos

de auditoría en el sector público dice el control externo tiene al igual que el interno limitaciones como la falta de medios para abarcar

el amplio ámbito de control la aplicación efectiva

requiere disponer de información regular y suficiente que permita el control y seguimiento de las cuentas de todas las administraciones públicas uno de los debates en plenario de ese congreso se titulaba nuevos requerimientos para el ejercicio del control en el marco de equilibrio presupuestario

y su última conclusión fue esta las necesidades de control ante estas demandas de mayor actividad y alcance se concluye que son entre otras

económica a tiempo y que no permite tomar

colaboración entre distintos niveles de control cooperación y colaboración de auditores privados con participación en las auditorías públicas concluirán con nuestro grupo parlamentario en que hacer una restricción vía mandato parlamentario es sencillamente

una ley en este mismo parlamento y luego mediante mandato parlamentario pretendemos restringir lo establecido por ley

y aprobada con un amplio consenso de esta cámara lo que se intenta es impedir y poner trabas al ejercicio de control interno tan necesario en estos tiempos la ley catorce barra mil novecientos noventa y cuatro contempla el ejercicio del control interno

contratados al efecto el parlamento tiene su propio ámbito de control que es el externo y para ello encarga los trabajos al tribunal de cuentas quiere también interferir

con qué objetivo qué es lo que se quiere lograr otra vez

que mediante mandato parlamentario se intente restringir lo que la ley

una excusa perfecta para arremeter para montar contra el pnv y en ese ánimo cómo no han encontrado voluntarios eh bildu siempre dispuesto a secundar cualquier

permanente incógnita de upyd qué harán ustedes

sin valorar lo absurdo de la iniciativa todo sea contra el pnv

todo sea la negación todo sea poner palos en las ruedas

ustedes creen que la gente les creerá cuando digan que tienen voluntad de colaborar

dijo que solo dedicaría un día a mirar hacia atrás el pnv se comprometió con la ciudadanía en primer lugar nada más entrar al gobierno

para saber la situación real y analizar la deuda acumulada del gobierno y sus sociedades públicas el pnv se comprometió la ciudadanía y el gobierno ha realizado lo prometido cumpliendo a raja tabla

vigente díganos qué problema ven ustedes

muchas gracias presidenta la historia de esta iniciativa

su origen efectivamente hace más de un año y creo que se recrudece

precampaña electoral vasca por aquellos tiempos

trata de lanzar la idea de que pudieran existir determinadas desviaciones en las cuentas del anterior ejecutivo el partido nacionalista vasco

de sembrar sospechas sobre la gestión del gobierno lópez como elemento de agitación electoral

evidente que si echamos la vista atrás todos podemos recordar perfectamente el partido nacionalista vasco anunció entonces que encargaría una auditoría externa

las elecciones el partido nacionalista vasco ya en el gobierno

mira para atrás y recuerda una de sus promesas tenía que encargar una auditoría externa para analizar las cuentas del ejecutivo lópez

porque ya ha alcanzado su objetivo de lograr el gobierno

encargar una auditoría externa de menor alcance que el inicialmente propuesto para cubrir el expediente

pero que tiene como objetivo insisto hacer ver en ese momento que cumple su promesa electoral bien el coste

euros en nuestra opinión tal cosa es una utilización injustificada e innecesaria de los dineros públicos ahora efectivamente digamos que contraataca el señor txarli prieto

el grupo socialista presenta esta iniciativa más política que técnica en nuestra opinión aunque también es técnica

recordar al gobierno actual que el dinero público es de los ciudadanos

pretende también recordar los hechos acontecidos en estos últimos meses que el señor prieto desde esta tribuna también ha descrito

el grupo nacionalistas vascos se agarra a lo que dice la ley pero en nuestra opinión el grupo socialista sin contradecir la ley va más allá y le exige que en el supuesto de recurrir a servicios externos para aquellas funciones lo comunique previamente al parlamento vasco para que este se pronuncie

y así lo entendemos nosotros no dice que no tenga derecho a recurrir a servicios externos para realizar esas funciones pero le pide que lo comunique

eso es lo que está escrito en la proposición no de ley del grupo socialista que el parlamento vasco se pronuncie

dice que el parlamento vasco pueda pronunciarse insisto al menos así lo entendemos nosotros y si lo entendemos así y entendida así

escuchado sin que quizás pueda impedir al gobierno que pueda realizar esas auditorías externas entendida así esta iniciativa a nosotros nos parece
y por eso votaremos a favor de esta iniciativa gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

muchas gracias señora presidenta no pensaba yo que podía dar tanto de sí este punto del orden del día

porque cuando alguien dice en lo primero que propone que se cumpla la ley las enmiendas de los que enmiendan dicen que se cumpla la ley

y todo el mundo dice que se cumpla la ley para luego terminar diciendo pero en este otro puntito vamos a incumplirla pues uno no termina de entender exactamente por qué sí lo entiendo yo le entiendo perfectamente al partido socialista por qué está aquí

me tiene que entender a mí usted me dice que el pnv hace un año se inventó un problema

digamos que aquí inventarse problemas lo estamos viendo todos los días por parte de todos los grupos por lo tanto

pero es que ustedes se están inventando problemas todos los días y a todas horas nosotros no tenemos ningún problema en que

a que acuda a los servicios de los que dispone vamos no es que no tengamos ningún problema es que está obligado a hacerlo no es que el gobierno vasco tenga que acudir a sus propios servicios es que esos servicios están obligados a actuar los servicios propios del gobierno vasco y también los del tribunal vasco de cuentas

del gobierno a acudir no ni es un mandato que se le va a dar hoy aquí en este parlamento es una obligación legal del gobierno y de los propios servicios internos del gobierno y externos del tribunal vasco de cuentas yo digo por centrar un poco lo que se pedía aquí

y luego lo que se ha planteado segundo auditorías privadas vamos a ver es que este gobierno todos los gobiernos

es que este gobierno está obligado por ley a hacer por lo menos yo calculo que un mínimo de cien al año

que se reciben en este parlamento entonces si un gobierno está obligado a hacer esas auditorías privadas

hechas por funcionarios por lo visto son muy malas y no valen a lo mejor hay que quitarlas y suprimirlas

y todo lo a lo mejor hay que dejar de hacer auditorías privadas por parte de todas las administraciones públicas en todos los organismos por ejemplo del sector público vasco entonces me gustaría aquí que alguno de ustedes que están con este discurso

es evidente que somos partidarios de que se hagan todas las auditorías que legalmente está obligado a hacer el gobierno públicas y privadas y además si cualquier gobierno estima que hay que hacer más o que quiere hacer más

será más transparencia y sabremos mejor en qué se gasta el dinero de los ciudadanos

que si la auditoría se hace sobre los datos que ya tiene el gobierno y el gobierno para ese viaje no hacía falta auditoría

para nada pero esa es la función de este parlamento criticar ese gasto inútil

hacer cualquier auditoría externa de todo el gobierno tenga que venir a este parlamento a que este parlamento haga qué según el partido socialista

para que nos pronunciemos según bildu para que nos expresemos

en qué a favor en contra vetamos

la responsabilidad es de estos señores y mi función como parlamentario es velar que se gasten adecuadamente el dinero de los ciudadanos y criticarles

como lo han hecho en este caso con esa auditoría pero desde luego lo que nosotros no entendemos es por qué el gobierno o nosotros aquí tenemos que autorizar o no una cosa a la que el gobierno está obligado a hacer por ley en el noventa y nueve por ciento de las ocasiones no tiene ningún sentido

qué va a hacer el gobierno incumplir la ley porque este parlamento le dice ahora no antes de cumplir usted la ley vamos a pasar por el parlamento para ver si

sí no o medio pensionista para nosotros no tiene ningún sentido y por lo tanto como creemos que aquí todo el mundo está empezando a perder un poco el norte

y nos abstendremos porque si somos partidarios de que se cumpla la ley eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandan

sí señora presidenta nosotros no estamos

sería absurdo plantearse objetivo nosotros lo que estamos en contra es de que este gobierno como consecuencia de un calentón

entonces candidato señor urkullu haya dedicado veinte mil euros a una auditoría que es

de traca de barraca que lo dice hasta la misma auditoría porque ni tan siquiera es una auditoría este es el problema ni tan siquiera hay una opinión en la auditoría y deja al albur de cada cual que interprete lo que le da la gana sobre la base de unos datos que han tenido que ser suministrados por los propios funcionarios oiga esto es malgastar

y este es el precedente que ha creado este gobierno y lo ha creado

o fíjense si sin ninguna necesidad que como he señalado en mi intervención anterior

por un buen comportamiento socialista en la formación del nuevo gobierno nos dijeron ustedes

que no hace falta que se haga esta auditoría en fin a un gobierno campeón de transparencia

nacionales e internacionales al que puso en marcha la transparencia que había que haber puesto por directivas europeas desde el año dos mil tres y por directivas de aquí desde el año dos mil siete y que tuvo que llegar este gobierno en dos mil nueve para ponerla en funcionamiento en

preocuparle una auditoría pues no

eso es lo que nos preocupa por eso hoy este gobierno tiene una auditoría que no necesitaba

que sí necesitaban y eso entra en las duplicidades eso entra en el malgasto del dinero público

eso entra en gastar

para esto y oiga si se pueden hacer desde lo público servicios de auditoría o de lo que fuere hay que hacerlo desde lo público primero hay que utilizar los recursos propios primero hay que utilizar a los funcionarios hay que utilizar al tribunal vasco de cuentas de la misma forma que este

sanidad o tiene que dar educación y lo tiene que dar desde lo público también tiene que dar transparencia y cuentas desde lo público y solamente cuando esté agotado lo público

cuando sea insuficiente lo público es cuando se puede ir a lo privado pero claro tenemos un precedente

esta cuestión y será razonable que el parlamento que es quien le controla

y le diga pues mire va a tener que venir aquí a proponernos las auditorías y ya veremos cuál es la opinión del parlamento y luego

y este es el planteamiento de la propuesta que nosotros traemos aquí claro y por eso nos parece bien como le he dicho también en la primera intervención

apura y hace mejor ese control cuando llegue aquí con más datos para poder tomar la decisión y por lo tanto cuando se ponga a votación también la apoyaremos y por supuesto agradecemos su disposición a apoyar la nuestra igual que la del señor maneiro que ha entendido perfectamente cuál es el sentido de la

le agradezco doblemente por el apoyo y por la explicación que ha sido extraordinaria señora gorospe en fin con esto de las personas de dar pena de vienen todos a por nosotros en fin ha habido un momento que no he sacado el pañuelo porque ya no llevo no se usa y el kleenex me parecía poco importante pero

a dar tanta pena porque no la va a dar usted es una mujer fuerte y guerrera y por lo tanto por mucho que diga todos vienen a por nosotros no ustedes se someten al control de este parlamento

incluso en fin plantearían si no reconocieran un acercamiento hacia la mayoría y esto

que tienen por ir buscando complicidades buscar complicidades es también reconocer errores luego no nos venga usted con la cantinela de que este gobierno gasta lo que tiene

lo que primero que hizo fue endeudarse nada más llegó que era lo primero que criticaba del gobierno anterior en fin

seguir contándole las aventuras y desventuras en las que ustedes están metidos pero desde luego como he dicho antes esta es

un gobierno que ha hecho una nefasta gestión de este recurso público y el cual se ha ganado el control de este parlamento y por lo tanto espero que salga adelante eskerrik asko

para ser este un debate de pérdida de tiempo creo que lo ha aprovechado bien decirle que de lo que aquí hemos venido a hablar

el sistema de auditoría usted nos ha contado de todo pero tampoco nos ha llegado a explicar en ningún momento a qué se debieron

y tampoco por lo que se ve ha leído la enmienda de modificación que se realizaba desde euskal herria bildu a la propuesta inicial del partido socialista de euskadi

es de esa famosa auditoría de la que se hablaba en campaña electoral

mediante la cual el pnv decía que iba a vamos iba a destapar aquí uno de los mayores pufos que podía haber dentro

se demuestra que ha sido la propia gestión del pnv que no viene aquí

por cuál es nuestro voto ya pasó una vez y vuelve a pasar le voy a explicar por qué nosotros vamos a votar lo que vamos a votar primero porque lo hemos decidido en conciencia

y segundo porque nos da la gana y

ni qué pensar eso que les quede claro y por otro lado cuando hemos hablado de angulas perdón auditorías también hemos sacado en varias de esas auditorías en dos de ellas ya se han sacado varias cosas que sí que parecen que son relevantes en una de ellas descubrimos

famosas para celebrar el qué contratos con incineradoras diputación foral de gipuzkoa primera en la segunda una compra de puros por valor de dieciséis mil euros lemoa que ya se puede fumar en lemoa para

repartirá puros a todos los alaveses y alavesas que vengamos a disfrutar de la bajada de celedón pero es que cuando usted ha venido directamente a atacar y creo que se ha pasado de frenada cuando directamente ha ido a por la banca eh bildu en vez de lo que se proponía en la enmienda o en la proposición no de ley que presenta el partido socialista de euskadi ustedes tienen bastante más de callar y vuelvo a decir

venir aquí con bastante mayor tranquilidad y menos orgullo ya que ustedes tienen de todo

lo primero puros eskerrik asko lópez de munain jauna

tortuoso camino será solo si ustedes quieren

porque nosotros vamos a hacer este camino y desde luego si todos ustedes quieren será placentero

su iniciativa yo llevo su iniciativa aquí salbuespen gisa

señor prieto usted dice porque ni tan siquiera da una opinión es que usted en su justificación

con un montón de errores sin saber ni tan siquiera qué es lo que era el documento qué ponía y cuál era el objeto lo que pasa es que a ustedes lo que les molesta es que en una hojita

así se vea reflejada la deuda que se ha dejado

de la administración general organismos autónomos entes sociedades públicas y fundaciones

en total eso es lo que duele en cuanto a las auditorías señor maneiro plantea usted

sabe lo que pasa que yo no sé cuál sería cada uno juzgará el origen de una forma o de otra lo que le puedo asegurar

son absolutamente técnicas y no tenemos más que ir a la memoria de ejecución del presupuesto del dos mil diez y del dos mil once donde en el objetivo número seis del programa economía y gasto público vemos por ejemplo que en el año dos mil diez se hicieron sesenta y cuatro informes de auditorías realizados por firmas independientes

también se hicieron ciento noventa y siete informes de auditoría realizados por firmas independientes correspondientes a sociedades no públicas y fundaciones participadas por la administración vamos a la memoria de justificación de ejecución del presupuesto de dos mil once y nos encontramos con que entre otros sesenta y cinco informes

cincuenta y seis informes de recomendaciones doscientos cuatro informes y todo esto con firmas independientes y ustedes

pretenden y usted pretende apoyar la iniciativa de ps y bildu que no firman para que usted también apoye y quieren que en adelante todo eso aunque sean de tres mil euros tenga que pasar por este parlamento

tengamos que pronunciarnos y dar nuestra opinión al respecto para que pueda llevarse a cabo

ustedes quieren que la administración pública sea ágil porque esto desde luego no va en ese sentido mire transparencia hablaba usted sabe lo que pasó con la transparencia

legislatura anterior transparencia internacional la ong hubo dos test que se hicieron por transparencia internacional la primera

obtuvo cincuenta y siete coma cinco puntos después el año dos mil doce obtuvo noventa y siete coma cinco puntos más cuarenta puntos a nosotros nos extrañó

comenzó a solicitar información al gobierno sobre que se había enviado a la ong transparencia internacional qué es lo que pasó pues que rellenó mal el gobierno el primer test qué raro verdad

en relación con lo que otro gobierno había hecho porque si el test inicial se hubiera rellenado bien pues claro se hubieran conseguido ochenta puntos sobre cien solo con rellenar bien el test en cuanto

toda la información está aquí sabe usted en la legislatura anterior cómo nos enterábamos del déficit pues con la información que mandaba desde madrid el gobierno no por el gobierno vasco el problema es como le decía los datos que aquí hay que ustedes han dejado una deuda diez veces mayor a la recibida

era por la buena herencia que ustedes recibieron eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

muchas gracias señora presidenta muy brevemente señor prieto pero si usted tiene toda la razón del mundo y todo el derecho del mundo

se lo he dicho desde el principio discrepamos entre otras cosas porque no estamos ni somos el gobierno ni estamos para entorpecer

lo que el gobierno legalmente tiene que hacer por lo menos eso lo entendemos

dese cuenta usted que el año anterior ustedes dejaban el gobierno de españa y decían que cumplían todos los criterios de déficit y resulta que no cumplían ninguno con lo cual pues es evidente que cualquier otro gobierno que sustituye a un gobierno socialista parte ya

de que las cuentas probablemente no estén como dicen que están

en este caso parece ser que sí estaban y muy probablemente se debió a que esas leyes de presupuestos del gobierno socialista pues también las aprobábamos nosotros y tenía una serie de controles legales incluso a la hora de

de la deuda cosa que en un principio al gobierno no le parecía bien o no le gustaba mucho pero conseguimos convencerles de que era una cosa buena controlar

yo no les voy a decir nada más nosotros nos oponemos a que pasen por este parlamento más de doscientos no sé si autorizaciones

sobre cada una de las auditorías que el gobierno está obligado legalmente a realizar

que no nos hagan perder mucho tiempo quizás deberían de haberlo matizado en hacer una comisión especial para este tema

señorías señor lehendakari como ustedes saben el año dos mil ocho se aprobó por mayoría en las juntas generales de gipuzkoa

en ese documento se prevé una serie de infraestructuras que cierran el ciclo con la planta

y que incluye una serie de objetivos en el tiempo y con el objetivo de aumentar las tasas de reciclaje en línea con las normativas europeas

sin un modelo de gestión de residuos concretos solo sabemos en aquel entonces que estaban en contra de la planificación prevista por la normativa que les acabo de mencionar como siempre en contra de todo como siempre en los temas de gestión sin alternativas reales

eh bildu en gipuzkoa dice no a la planta incineradora pero

a la imposición de un determinado sistema de recogida el conocido como puerta a puerta y además dice sí a esa imposición sin contar con la voluntad de la ciudadanía

ha reaccionado los guipuzcoanos se han enfrentado con plataformas locales que se oponen frontalmente también a la imposición del puerta a puerta en sus municipios hasta ser capaces de haber recogido más

en los pueblos donde se ha intentado imponer este sistema

e irún por ejemplo ya que suman ambos más de un tercio de población de toda la provincia este dato me parece relevante para poner en valor

firmas que se han recogido en pequeños núcleos de población a modo de ejemplo

en el que más del noventa por ciento de los que participaron rechazaron frontalmente el sistema de recogida del puerta a puerta dando por cierto una lección de participación ciudadana

nunca aplicada estos dos últimos años de mandato foral y municipal dando un ejemplo también

de la voluntad popular estos años tengo que decirles también que el partido popular en los diversos presupuestos municipales así como en las juntas generales de guipúzcoa ha venido proponiendo

selectiva de materia orgánica con el objetivo de revertir los malos datos del año dos mil doce y es que

por los guipuzcoanos cuál es la realidad la realidad es que en europa no se entiende

la energía el dato más preocupante es que con independencia de los sistemas de recogida

la ausencia de infraestructuras de gestión en el territorio condena directamente al vertido de más de dos tercios de los residuos generados sin poder darles adecuado que es lo que exige la unión europea que es convertir los residuos en un recurso energético en dos mil doce

es decir ese sesenta y seis coma cinco por ciento fueron a parar sin tratamiento previo

igual que ahora con una planta de compostaje lapatx en azpeitia las de selección de envases ligeros en urnieta y legazpi

en definitiva la directriz de europa en el sistema integral de gestión de residuos urbanos es muy clara reciclaje

rechazando de plano el uso de vertederos como dato también a poner sobre la mesa los países en europa que más reciclan son los que a su vez más incineran o valorizan por ejemplo alemania

o bélgica el problema de la gestión de los residuos es una cuestión de tipo

que lleva años de discusión y que costó por cierto mucho esfuerzo acordar después de años de gestión de discusión y de debate en guipúzcoa por fin fuimos capaces de acordar un modelo

pero eh bildu lo ha querido convertir esa es la realidad en un problema de carácter político

donde llevan décadas de ventaja en estos temas es que hay que invertir y apostar también por la educación

nunca en ningún caso por la imposición en definitiva hay que seducir al ciudadano

no como un problema sino como una oportunidad como una necesidad no como una imposición estamos hablando también

con lo cual nuestro requerimiento único y prioritario también es el cumplimiento de la legalidad de lo acordado podemos entender la discrepancia

hay que activar el mecanismo correspondiente de modificación de la normativa cuya competencia en su faceta de planificación integral como ustedes saben corresponde a las juntas generales

la ley general de protección de medioambiente del país vasco otorga a los territorios históricos

de la gestión de residuos a través de planes forales por lo tanto la competencia está clara eh bildu quiere arrebatársela y de hecho se la ha arrebatado

y si se quiere cambiar se tiene que proponer y sacar adelante una modificación de la norma foral vigente lo que es lo mismo que decir que cumplir la legalidad y ahora mismo cuál es la realidad a la que estamos sometidos y que padecemos los guipuzcoanos pues que no tenemos un sistema alternativo ni existe tampoco voluntad de cumplir la normativa vigente y lo que es más impresentable no tenemos suficientes infraestructuras para absorber la cantidad de residuos urbanos que se generan en guipúzcoa mientras tanto eh bildu el gobierno foral

se encarga de perder el tiempo y el dinero de todos los guipuzcoanos

es que un sistema como el puerta a puerta

se impone en los municipios donde también gobierna eh bildu

contra la voluntad mayoritaria del pueblo con lo que no contaban con lo que no contaban es que las cosas han cambiado

con lo que no contaba eh bildu es con la reacción del pueblo

contraria del pueblo ante la imposición y por lo tanto lo que pedimos en este pleno lo que solicitamos en esta cámara

del parlamento a los ciudadanos guipuzcoanos que están siendo atropellados por la imposición del gobierno de bildu no podemos abandonar a quienes se están oponiendo al puerta a puerta a los que además asiste la legalidad

el sentido común ese que lleva a rechazar un sistema

que del veintiuno que consiste y se resume en recoger la basura con unos pinchos de acero puestos en la calle eso es el puerta a puerta y esa es la imposición

a la que eh bildu somete al pueblo vasco en este caso la imposición que somete eh bildu a los guipuzcoanos hay un acuerdo una enmienda de transacción acordada

con lo cual al menos hoy los guipuzcoanos tendrán un soplo de optimismo y es que hay una mayoría política en euskadi que defiende sus derechos y que desde luego está dispuesta a respaldarles

nuestros pueblos y ciudades llevan tiempo destinando los recursos económicos municipales

entre los múltiples servicios que los ayuntamientos ofrecen por ser de ámbito de competencia local está la recogida de los residuos urbanos son muchos los años durante los cuales han sido los municipios la plataforma más cercana directa y cercana

programas y actividades basadas en la agenda local veintiuno la labor pedagógica el desarrollo de una cultura colectiva y la sensibilización hacia los temas medioambientales han sido una ardua y constante tarea en la que se han involucrado diversas generaciones

las mejoras urbanísticas de nuestras localidades y el desarrollo y la rehabilitación de infraestructuras básicas nos van permitiendo adquirir día a día conciencia de la necesidad de proteger y cuidar el medio ambiente este compromiso colectivo por la sostenibilidad también ha tenido su contribución en la gestión de los residuos urbanos

cuando depositábamos las basuras en el suelo hasta la actualidad los avances en la higiene y la calidad urbana de nuestras calles y plazas se han producido de la mano de los contenedores cerrados a la colaboración ciudadana la introducción de contenedores específicos para las diferentes fracciones de residuos nos han permitido mejorar las tasas de recogida selectiva

y el deber ciudadano de incrementar los umbrales de reciclaje de residuos hoy

acerca de la necesidad de dar un paso más en la mejora del sistema de recogida selectiva con el objetivo de alcanzar mayores cotas de sostenibilidad medioambiental con mayores niveles de reciclaje pero también se ha hecho evidente la contestación social a la imposición del sistema de recogida puerta a puerta

está provocando el rechazo mayoritario en gipuzkoa con la constitución de diecisiete plataformas contra el puerta a puerta

la realización de múltiples protestas y manifestaciones el próximo día treinta y uno tenemos una en villabona y hasta la celebración de una consulta ciudadana en legazpi

un mayor consenso entre la ciudadanía y no por aquel que provoca un rechazo

por eso proponemos la implantación del quinto contenedor para la recogida de materia orgánica como sistema que permite el incremento de los umbrales de reciclaje

ha sido decir no a la imposición de este sistema de recogida de residuos

hace más de treinta años en el nivel de higiene y salubridad de nuestros pueblos y ciudades poniendo entredicho

los socialistas os tenemos una alternativa frente al sistema de puerta a puerta que es la de respetar los contenedores ya existentes

contenedor hemos defendido y defendemos que el puerta a puerta no es único sistema que permite el crecimiento de los umbrales de reciclaje

es la implantación del quinto contenedor o contenedor marrón porque está demostrado que es un sistema más limpio sostenible y eficaz

con restos de comidas en las aceras con olores en las casas y con cubos que limpiar este sistema es más caro

implantado durante muchos años y que han sido pagada por todos los contribuyentes y es un sistema incómodo porque impone un determinado calendario invadiendo la intimidad

en un almacén de residuos y se establece de algún modo un control social innecesario resulta además evidente que la colocación de los pinchos de los colgados

por eso exigimos a bildu que deje de imposiciones basadas en intereses partidistas y gobierne para la ciudadanía guipuzcoana y no contra ella

sobre las movilizaciones ciudadanas que se están haciendo cada día más relevantes tiene que gestionar los ayuntamientos sobre la base del interés general y no del partidista la ciudadanía

a los que hay que prestar servicios y no gobernar contra ellos bildu tiene que plantearse muy en serio que el desasosiego el malestar y la indignación

la convivencia en nuestras calles y pueblos bildu no puede seguir enrocándose

cuando la ciudadanía está atravesando una crisis económica y social sin precedentes la imposición como herramienta de gestión pública municipal no es de recibo en una sociedad democrática como la nuestra y la utilización conlleva

al deterioro de las relaciones de nuestros vecinos y vecinas con su ayuntamiento rechazando los servicios que se les propone al no sentirse vinculados a una gestión pública

la imponen contra su voluntad bildu debe reconsiderar su decisión

que paga las tasas de basuras por un sistema como el puerta a puerta que ni aprecian ni valoran bildu tiene que gestionar los escasos recursos económicos que disponen los ayuntamientos
con eficacia y eficiencia y hoy por hoy el puerta a puerta no es un ejemplo de buena gestión municipal muchas gracias eskerrik asko